buenas tardes a todos tal día como hoy del año mil novecientos ochenta eta asesinó en santurce a antonio fernández trabajador del puerto

la bancada de eh bildu todavía no ha condenado este asesinato durante años este parlamento ha sido testigo de la construcción de un proyecto político imposible ilegítimo y elitista el proyecto de un país vasco independiente un proyecto euskadi que se ha construido sobre el chantaje el odio a españa y a los españoles

e incluso el asesinato mientras que unos en las calles de toda españa movían el árbol a base de violencia muchos de ustedes la clase política vasca recogían nueces pero el proyecto separatista que tanto buscan está condenado al fracaso tanto por su idea misma de obligar a los vascos a renunciar a una parte de su identidad como por los métodos que han utilizado para su realización la muerte el odio y el chantaje la razón de ser de vox y el motivo por el que más de diecisiete mil quinientos vascos nos han fiado su voto

los que lo han inyectado en la sociedad vasca y los que con su silencio se han convertido en cómplices del separatismo y de la violencia

ha impuesto un cordón sanitario a una fuerza política que ha logrado legítimamente representación en este parlamento gracias a los votos de miles de personas se nota que no conocen a vox cuanto más insulten y silencien a nuestros votantes más creceremos

sino a los miles de vascos que libremente defienden las ideas que yo represento ejecutan en esta legislatura

y de intensa actividad criminal de la banda cordones sanitarios contra el terrorismo y contra la bancada donde se sientan tres terroristas sí

esa de la que tanto saben sus partidos al pnv le suena el caso margüello

y nadie debería de olvidar aquellas décadas de extorsión a empresarios ejercidas por herri batasuna y su entorno

lo han suspendido de forma clamorosa han demostrado que su idea de democracia es la del impuesto revolucionario

de pensar y hacer lo que quieras siempre que coincida con lo mío

ha sido tan baja como la obtenida ante la prueba que ha supuesto la pandemia que aún padecemos suspenso tan rotundo que es un hecho que el actual estado de las autonomías ha quebrado cuál es el resultado tras seis meses de pandemia diecisiete protocolos sanitarios vueltas al colegio absoluta carencia de liderazgo profunda descoordinación un insoportable número de personas fallecidas y dos millónes de vascos abandonados a su suerte a quienes ustedes y su consejera no han tenido reparo en responsabilizar de los malos resultados de su penosa gestión un ejemplo de ahora mismo el bochornoso espectáculo que han protagonizado la ministra de educación y su consejera uriarte señor urkullu miles de padres madres de alumnos

decenas de miles de personas que prestan servicios en el ámbito educativo

de organizar de preparar de diseñar escenarios seguros indefinición absoluta porque ni ministra ni consejera han aparcado sus vacaciones para trabajar

una irresponsabilidad más que pone en peligro el derecho de nuestros hijos a una educación

en contagios en desorganización en opacidad en imprevisión el balance de su gestión del coronavirus es tan catastrófico como el de sus socios de gobierno central por eso este mismo mes vox tratará de acabar mediante la moción de censura con el gobierno social comunista al que ustedes instalaron en moncloa y que no ha llevado a los españoles más que a la enfermedad y la ruina

la crisis económica a la que nos enfrentamos va a dejar absolutamente desprotegida a la mayor parte de la ciudadanía vasca y su modelo político no va a solucionar ninguno de sus problemas pues nos lleva a miles de autónomos y empresarios en la ruina familias sin recurso alguno desempleados

jóvenes y no tan jóvenes sin perspectiva de futuro empresas con un futuro incierto en un contexto de permanente incertidumbre

aernnova mercedes que tiemblan ante un gobierno bicéfalo pnv psoe que hoy dice a para mañana decir b

y lejos de concentrar sus esfuerzos y energías en resolver tan dramática situación ustedes siguen con su ancestral empeño de la secesión

hoy ya son pocos los que asocian al pnv con buena gestión usted como su partido y su aliado pedro sánchez son trileros de barrio y oportunistas de salón y todo ello sin recontar el paro encubierto de los erte los futuros ere que van a provocar una avalancha

cómo puede ser así en una de las zonas más ricas del país en realidad qué significa esa apuesta por lo social que tanto vocean ustedes en qué se escapan nuestros recursos

en duplicidades administrativas y en instituciones que son chiringuitos como emakunde

en medios de propaganda como la etb la televisión autonómica de españa más cara por habitante en un modelo territorial ridículo y muy costoso basado en el enfrentamiento entre territorios para un control férreo

como parte de su proyecto de la ilusoria euskal herria unida en el fomento

indiscriminada caldo de cultivo de guetos que afecta de forma directa e insoportable a los trabajadores les contaré un secreto además los vascos no cobran de media cincuenta mil euros al año como su medio centenar de asesores

en un sistema de cronificación de la pobreza y de efecto llamada a la inmigración ilegal

necesitan oportunidades reales de lograr una ocupación remunerada no un interminable elenco de cargos públicos y un séquito de personas colgadas del poder

necesita que ustedes se pongan a trabajar y necesitamos que nos dejen trabajar lejos de buscar la justicia social la solidaridad y la igualdad su proyecto de país

pero esta mentira no puede durar eternamente estoy aquí vox está aquí para despertar de este fatal letargo a cuantas personas estén dispuestas a escucharnos y son más de las que ustedes creen o manejan en sus manipuladas encuestas

señora candidata usted es la antítesis de lo que españa representa usted representa el odio a sus conciudadanos

más recalcitrante que ha existido en europa en los últimos cien años

una abominable lucha entre sexos el ecologismo falaz la crueldad y la intolerancia y siguen sin pagar su deuda con más de ochocientos cincuenta personas asesinadas por eta algo que jamás les vamos a perdonar

no solo no les vamos a votar como candidata a lehendakari no vamos a apoyar un solo documento que venga con sus siglas hb o cualquiera que elijan nuestro principal objetivo en este parlamento es que ustedes desparezcan del mapa político y legalizar a los herederos de eta es la acción más democrática que puede hacerse en este país

nosotros no olvidamos no olvido siempre me tendrán enfrente en memoria y por la dignidad de las miles de personas a las que han causado un daño irreparable es una profundísima injusticia que ustedes tengan representación aquí en esta cámara señorías

un país del que también fueron padres ilustres vascos y el anhelo de acabar con españa es lo único que une a las cuatro formaciones que han suscrito el vergonzoso cordón sanitario con el que pretenden acallar a miles de ciudadanos nuestro proyecto pese a las falsedades de su propaganda está basado en la libertad la solidaridad y la unidad es un proyecto para resolver problemas reales por ello defenderemos las ideas por las que hemos sido elegidos poner fin a años de adoctrinamiento en el odio a españa y a los españoles mediante la imposición

para devolver las competencias de sanidad y educación a la nación una urgencia tras el fracaso del estado de las autonomías en la gestión de la actual pandemia

acorde a las necesidades económicas y sociales reales inmigración integrada en nuestra sociedad sin guetos inmigración respetuosa con la sociedad que le acoge

tenemos que proteger las familias decirles también que a pesar de su antidemocrática reducción de mi tiempo de intervención a un tercio diez miserables minutos me ha sobrado tiempo para cantarles esas verdades que otros con treinta minutos no les dicen en definitiva

se vuelva a escuchar después de tanto tiempo una frase viva españa eskerrik asko

señora presidenta señorías dicho esto también quiero recordar al conjunto de nuestra sociedad

sus esperanzas y su futuro quienes deben volver a protagonizar la vida política de nuestra comunidad este compromiso y la voluntad de servir a todos nuestros conciudadanos guiarán la actuación de nuestro grupo parlamentario el partido popular y ciudadanos va a ser así desde el primer día

un pleno con poco suspense y ninguna incógnita de hecho ya sabemos hace días

cuenta con los votos necesarios para ser investido de nuevo como lehendakari y sabemos que la oferta de bildu supuestamente alternativa no los tiene pero además en términos democráticos no es posible poner en plano de igualdad a ambos candidatos ustedes señora iriarte han llegado a la legalidad formal

no alcanzarán la democracia les queda ese puente por cruzar y no hay excusa en democracia que justifique su negativa a hacerlo por tanto

y no representa algo que podamos desear para el futuro de esta sociedad aprovecho para decir que nosotros sí que recordamos a las víctimas del terrorismo de eta que forma parte de la memoria y la historia de euskadi y del resto de españa y que tanto contribuyen a la defensa de la paz

y recordamos muy bien la entrega y el sufrimiento en defensa de las libertades democráticas también de las fuerzas de seguridad como víctimas del terrorismo

a los que algunos debemos la vida en esta cámara y a los que ustedes sin disimulo alguno

todo mi afecto apoyo al cuerpo de la guardia civil y por lo tanto creo que he sido claro y no debo desperdiciar más el tiempo con esta candidatura así que

a usted ahora señor urkullu usted será ya esta tarde lehendakari

y reeditará su pacto con los socialistas vascos visto lo visto en sus anteriores mandatos permítame que le diga que desde nuestra posición no es una buena noticia hay un riesgo alto de que estemos ante más de lo mismo que hemos vivido

reparto de sillones y debates identitarios fracasados apoyo

española y por tanto de la vasca propuestas de futuro que dividen y que enfrentan a los vascos una gestión fracasada marcada por la parálisis

y también por la corrupción y que finalmente queda retratada en la imagen grotesca que devuelven los espejos de zaldibar

anuncio por tanto que nuestro voto será en contra de su

en contra mediante la abstención que es el único modo en que nuestro singular reglamento o más bien la interpretación abusiva que de él se viene haciendo y que seguiremos tratando de cambiar en esta cámara permite oponerse a la investidura de un candidato en este parlamento vasco

a su investidura porque tenemos pocas esperanzas de que su desempeño mejore respecto a anteriores legislaturas

ni la negociación del nuevo acuerdo con el partido socialista invitan a confiar en un cambio positivo el riesgo

y la pregunta clave al final es la de la agenda estará su gobierno

de la agenda de los vascos o estará su gobierno al servicio de la agenda nacionalista como usted ha hecho hasta ahora y como señalaba para el futuro

la señora presidenta de la cámara en el primer minuto de la nueva legislatura y si prima como creo la agenda nacionalista cuenta ya con el servicio el silencio

a tragar con los intereses de pedro sánchez por delante de las prioridades y preocupaciones de los vascos a eso se lo contesto yo creo y usted también lo sabe que creo que cuenta con ello nada en su actuación

permite confiar en un futuro gobierno centrado en la agenda de los vascos que debería

y liderar a toda la sociedad vasca y no a una parte de esta sociedad para empezar

creyó usted innecesario reunirse con los diferentes líderes políticos

ese toque de soberbia al señor sánchez pero se ve que todo se pega entre socios la tradición dice que es una ronda para buscar apoyos

pero que también hubiera permitido sondear otras posibilidades de acuerdo al no hacerlo desprecia a los restantes grupos de la cámara pero sobre todo revela su desinterés

al servicio de la sociedad vasca eso sí que es un mal comienzo desde mi punto de vista todo indica tal y como se ha producido la negociación partido nacionalista vasco partido socialista que ha sido un paripé que como yo decía

y que denunciamos ya en su día el futuro ya estaba acordado desde antes de las elecciones que hemos asistido a una mera farsa demorada semanas en el tiempo hasta septiembre para captar solo el foco mediático

tanta urgencia electoral y ahora ninguna prisa por tener un gobierno plenamente operativo

y para rematar ese documento de bases que apenas aporta nada

intensas como fingidas negociaciones seguido además de un acuerdo de coalición rodeado de secretismo hasta hoy mismo y es que en pactos secretos parecen ustedes ser especialistas hemos conocido antes pactos y conversaciones secretas con el señor sánchez

que siguen en la mente de todos y la percepción en la calle es de burla a la sociedad vasca atónita ante el gran escollo

que es la supuesta dificultad de contar con una vicelehendakari socialista o una de cada socio

lógicamente y la señora mendia me imagino que será la segunda no sé qué decidirán finalmente pero yo le digo que la vicepresidencia no es un mero título la última que conocimos la señora zenarruzabeitia tenía docena y media de altos cargos en su

solo como vicepresidenta sería bueno que nos aclarase sus

porque multiplicar vicepresidencias no es barato y quizás

los vascos nos preguntamos pues con la que está cayendo para qué sirve todo ese juego de las sillas equilibrios internos del gobierno aparte

en el uso de este gobierno como agencia de empleo para el pnv y el partido socialista y por qué será que al comentar esto me he acordado de los mil asesores socialistas en moncloa todo ello señor urkullu

y con el trasfondo durante seis meses de caótica gestión en la lucha contra la pandemia de la covid diecinueve seis meses con el parlamento disuelto sembrados de dificultades para el control de gobierno de trabas para comparecer ante la diputación permanente de abusos reglamentarios

y de mínima rendición de cuentas aspectos todos ellos

en las últimas semanas por el gobierno ya en funciones y después de todo esto señor urkullu a partir de mañana la realidad seguirá

todos los vascos la realidad de miles de fallecidos por las pandemias y sus familias la angustia de quienes tienen a sus seres queridos viviendo en una residencia la realidad del crecimiento del paro los miles de personas en erte y ere

o los comerciantes que han bajado o están pensando en bajar la persiana la realidad de las incógnitas y temores de la vuelta al colegio

la vida laboral y familiar de algunos si los más jóvenes de la familia no pueden volver a las aulas como sabemos

realidad de nuestros jóvenes de nuestro talento mejor preparado que todos los domingos inundan estaciones de autobuses y aeropuertos que buscan fuera del país vasco un futuro laboral y unas oportunidades que aquí señor urkullu

debo decir aquí que también el uso político que hacen ustedes del euskera no ayuda ustedes lo convierten en un muro entre vascos y en una rémora a la vista está

y atraer el ajeno y de los dos estamos bastante necesitados como para despreciarlo y desperdiciarlo la realidad también de los rebrotes de los contagios de los confinamientos selectivos de las cuarentenas de nuevos fallecimientos cada día que salpican nuestra geografía y nuestras vidas

ustedes al parecer están como siempre exentos de responsabilidad alguna

digo yo que alguna alguna responsabilidad debe de tener usted su gobierno

al fin y al cabo hemos vivido en euskadi una de las peores situaciones en el país del mundo que peor

a la pandemia y ahora con los rebrotes seguimos entre los peores la diferencia es que aquí no vivimos el caos político y administrativo de cataluña ni la gestión lamentable por el gobierno central de un gran aeropuerto como es el de madrid ni la presencia

de temporeros como sucede en aragón entonces cuál es la explicación para que estemos como estamos pero hoy sin embargo

de autocrítica sincera permítame que se lo diga sin acritud ni por el drama que se vivió tampoco durante semanas

incapaz de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos ni por el abandono de los colegios a su suerte por un departamento de educación que ni está ni se le espera

o la vuelta escalonada eso sí como los centros buenamente puedan dicen ustedes es decir

las manos y esa falta de autocrítica es ya un mal inicio cuando viene usted a pedir la confianza de la cámara esa realidad que puede que sea aún más dura por sus consecuencias económicas y sociales dentro de unos meses como usted mismo ha repetido

en su intervención anteriormente es la que reclama su atención como gobernante

afrontarla es su primera y principal responsabilidad porque esa realidad es la que centra hoy todas las preocupaciones de la ciudadanía vasca

en este momento quiero comprometer también nuestro trabajo y esfuerzo de mi grupo para afrontar esa realidad nuestra voluntad de buscar acuerdos que permitan hacer frente a la pandemia y dejar atrás

sus devastadores efectos económicos y sociales también es nuestra responsabilidad desde la oposición sí hacer propuestas sumar tratar de dar respuestas a la angustia que hoy vive la práctica totalidad de nuestros conciudadanos para ello

y la de nuestro grupo mano tendida para acordar al servicio de la sociedad vasca

señalaré al menos una decena de materias para el acuerdo materias en las que creo que gobierno y oposición

debemos buscar puntos de encuentro y remar en una misma dirección pero debo advertirle también

es incompatible con otras cosas es incompatible con el doble juego con jugar a las dos mayorías en esta cámara no es posible trabajar los lunes

los martes con bildu a desarrollar una agenda solo para nacionalistas

buscando escenarios de ruptura constitucional impulsando su famoso nuevo estatus con los socialistas consintiendo tragando y colocados de perfil en esa cuestión

usted lo sabe defendemos la constitución y el estatuto defendemos el concierto y la foralidad y lo hacemos porque consideramos que constituyen el marco de convivencia y de libertades más adecuados para el entendimiento entre vascos y con el resto de los españoles

de que su nuevo estatus comienza por dividirnos y enfrentarnos a los propios vascos como ya lo hizo el plan de ibarretxe y por eso tuvieron buen cuidado en guardarlo en el cajón durante

que hemos vivido ese ha sido su juego en la pasada legislatura

en su acuerdo para formar el nuevo gobierno ese es un juego irresponsable contrario al interés de los vascos y que firmen un documento con socialistas

acotar sus diferencias en este tema tampoco nos beneficia en nada a los vascos es más señora mendia permítame que le diga que ustedes firmen un papelín con el partido nacionalista vasco no les librará de papelón el día

impulse este escenario de ruptura ni nos librará a los vascos de los efectos lamentables de ese doble juego como ya vivimos

famoso de ibarretxe quiero decirles además que tampoco se sirve al interés de los vascos con ese pacto de hierro en respaldo de sánchez y su gobierno con podemos

llevaron a pedro sánchez a la moncloa y después respaldaron su investidura

actual son ustedes responsables del peor gobierno de españa en uno de los peores momentos de nuestra historia

para el interés de los vascos llegar a acuerdos en esta cámara y hacer planteamientos

al señor sánchez y yo le invito a tomar esa senda por ejemplo afrontar la realidad económica y social que vivimos exige en este momento

más allá del treinta de septiembre hemos planteado llevarlos hasta el treinta y uno de diciembre

del año dos mil veintiuno eso daría alguna tranquilidad a muchas familias

permitiría a muchas empresas afrontar los próximos meses sin verse abocadas al cierre es más el interés de los vascos precisa de la

con motivo de la pandemia a otros sectores de la actividad primero fueron la hostelería el comercio el turismo ahora son sectores industriales

los que en septiembre se enfrentan a su peor escenario usted lo sabe recuperar la industria después del cierre requiere un esfuerzo titánico

un tiempo precioso hemos planteado este debate a la cámara

debemos tomar una posición conjunta ante el gobierno del señor sánchez en interés de los vascos como deberíamos hacerlo segundo acuerdo

a pesar de su apoyo al señor sánchez para oponernos a la incautación de los remanentes de las entidades locales singularmente ayuntamientos por el gobierno central mediante el chantaje inadmisible que ustedes conocen no se trata solo de defender la foralidad y

no se trata solo de lograr una excepción para el país vasco se trata de evitar solidariamente un expolio que atenta contra la autonomía local reconocida en la constitución española y que impide contar a los ayuntamientos

no hacerlo supondría anteponer los intereses del pnv y del señor sánchez al interés de los vascos y tampoco se sirve al interés de los vascos

sobre determinadas cuestiones pretendiendo que ahora no toca esta semana vuelve a la actualidad

con todo su rosario de corrupción irregularidades

por cierto que aquella chapuza haya restado capacidad

aparte de perjudicar la credibilidad de nuestra administración y es que la pasada legislatura algunos han descubierto que euskadi no es un oasis

limitado sin pudor alguno a un reparto de poder como le he dicho anteriormente

sin determinar responsabilidades políticas el caso de miguel con prácticas que la fiscalía comparó con las de la mafia

o tantos y tantos otros casos de los últimos años porque esta actitud

en corresponsables políticos de esa misma corrupción menos aún se puede olvidar zaldibar no solo debemos recordar a las víctimas de la catástrofe

debemos recordar los hechos saber qué pasó que falló por qué falló en zaldibar nosotros no tenemos la capacidad para impulsar una comisión de investigación aquí en la cámara como grupo único como solo un grupo que además todos sabemos que la mayoría del gobierno

ha repetido esta mañana pero debemos ir más allá en interés de todos los vascos debemos examinar nuestra política de vertederos conocer la gestión

los controles de los vertederos de residuos no urbanos como el de zaldibar es imprescindible hacerlo para prevenir otras situaciones similares para evitar que esto se repita en un futuro esta cámara debe hacer ese trabajo por ejemplo

esta es la tercera cuestión en la que creemos que se debe llegar a acuerdos entre gobierno y oposición aquí en este parlamento y que un ejecutivo responsable no debería eludir y ya le anuncio que es un debate que plantearemos más pronto que tarde hasta aquí

del nuevo gobierno que creemos incompatibles con el interés de los vascos pero decía antes precisamente

en este interés y hoy el interés de los vascos pasa ineludiblemente

y sus consecuencias en todos los ámbitos sociales y económicos de nuestra tierra es preciso rectificar tantos errores cometidos

tanto tiempo perdido durante la gestión de la pandemia la suya ha sido una gestión manifiestamente mejorable en el ámbito de la salud septiembre comenzó con los contagios disparados cerca de quince mil en agosto e incrementos preocupantes en el número de ingresos

pasando de ochenta y tres en julio a setecientos treinta y siete en agosto y en el de fallecimientos también

y con la atención primaria además sometida a una presión creciente mientras se multiplican las quejas por el deficiente funcionamiento de la atención telefónica no hay noticia de que ante segunda ola de la pandemia piensen contar con un verdadero comité de expertos en vez del de leales designados a dedo que constituyeron a toda prisa

en el tema de los rastreadores el desprecio cometido al rechazar la colaboración de la ume en los peores momentos para nuestra sociedad las residencias de ancianos vuelven a ser motivo de preocupación y de angustia

después de vivir situaciones terribles es imprescindible por tanto avanzar y hacerlo con rapidez hacia un verdadero espacio sociosanitario que evite

a arrimar el hombro como lo he venido exponiendo en primer lugar necesitamos alcanzar un pacto para reforzar la sanidad especialmente la atención primaria un pacto que revise la estrategia de atención primaria incremente los recursos humanos y materiales

pacientes de covid diecinueve como de pacientes crónicos en segundo lugar debemos acordar una nueva estrategia para la atención sociosanitaria

en las residencias y dé respuesta a las necesidades de una población cada vez más envejecida en nuestra tierra sobre esa base podremos evaluar el actual modelo residencial y tomar medidas para resolver las deficiencias detectadas

en el ámbito de la educación hoy a tres de septiembre el número de familias que no se aclaran

la conciliación del trabajo de los padres con los anuncios que se hacen desde educación preocupa a muchas familias la dificultad de contar con medios para

el retraso asombroso retraso debe mucho al intento del departamento de transferir la responsabilidad a los centros y los centros públicos como concertados o de educación especial

desanimados y a menudo incapaces de funcionar con las medidas a adoptar faltan medios recursos y financiación como vienen poniendo de manifiesto todos los días los medios de comunicación por no hablar de futuros perjuicios en el nivel académico de esos mismos alumnos

cómo se plantea su vuelta al cole o a la universidad en esto tampoco se puede esperar más somos conscientes de ello pero hacer frente al comienzo de curso exigencias y costes que a día de hoy no están resueltos por ello planteamos un acuerdo para reforzar las partidas presupuestarias destinadas a atender las nuevas necesidades de la educación en los centros públicos concertados y de educación especial

en nuestras universidades tanto en medios personales como materiales y de inversión también necesitamos un acuerdo para dar un decidido impulso a la digitalización

que no nos podemos permitir como sociedad debemos garantizar

a medios informáticos y digitales superando la brecha tecnológica que amenaza convertirse en una nueva fuente de desigualdad social e intergeneracional y con carácter general ya que he hablado de sanidad y educación es necesario el fortalecimiento del empleo en los servicios públicos esenciales que han resultado

un pacto que permita actuar con rapidez en esta materia contará con nuestra mejor disposición desde el primer momento

de lanbide el mayor fracaso todavía sin corregir de nuestra administración

colapso total no es fácil encontrar una valoración diferente

que no fueron capaces de aprobar en la pasada legislatura y que ha generado una situación insostenible y con los niveles de paro ascendiendo a cifras de la crisis de dos mil ocho

la lista del paro son ya casi treinta mil en el semestre de pandemia que llevamos

no hace falta insistir en la preocupación que autónomos comerciantes

representa y nos representa también para nuestro grupo en estos momentos por ello una vez más le mostramos nuestra disposición a acordar con urgencia la reforma de lanbide una reforma en profundidad que permita contar con un verdadero servicio vasco de empleo

su función clave en estos momentos y en el escenario previsible para los próximos meses

programas de ayuda y apoyo a autónomos comerciantes y pymes que eviten el abandono de la actividad y la destrucción de un mayor número de empleos a estos sectores les vendría bien conocer lo antes posible las cantidades provenientes de los fondos de ayuda de la unión europea

y vamos a recibir en esta comunidad en ese terreno también debe ser posible el acuerdo y llegados a este punto quiero subrayar que para nuestra coalición hay una prioridad ineludible las familias las familias vascas que precisan apoyo ayudas

en su día a día ese plan de apoyo a las familias debe ser compartido impulsado con toda brevedad superando la desidia de la anterior legislatura y le ofrezco desde ahora plena disposición a lograr ese acuerdo y

que está en la mente de todos la fiscalidad que también es un instrumento a emplear

a la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas nuestro marco de competencias es el que es pero yo le ofrezco nuestra disposición a negociar en el ámbito apropiado un pacto fiscal que facilite el tránsito de familias empresas y autónomos en los próximos años

voy terminando por último no porque sea menos importante creo que debemos ser capaces de dar un impulso a la

su gobierno hablaba de inversiones de miles de millónes de euros en esta materia para los próximos años sentémonos y acordemos cómo hacerlo impulsemos con urgencia programas de apoyo a la

y potencien nuestros centros tecnológicos y de investigación tan necesario en estos momentos

probablemente el número de nuestras discrepancias las discrepancias de su grupo y el mío de su gobierno y nuestro grupo sea mayor que el de nuestras coincidencias pero ya he recalcado antes que somos conscientes también de nuestra responsabilidad como oposición ante los ciudadanos y queremos creer que es posible

en tres aspectos distintos cuando el futuro se aborda desde duro presente como usted sabe en su mano está impulsar ese diálogo imprescindible dando prioridad responsablemente a la

escenario irresponsable abocado además al fracaso de más inestabilidad de más incertidumbre que representa o representaría

arratsalde on legebiltzarkideok es cierto que la constitución del nuevo gobierno vasco se da en una situación de excepcionalidad con pocos precedentes
pero pensamos que también es cierto que las enormes consecuencias socioeconómicas de la crisis provocada por la pandemia no son tan nuevas hacer frente a la pandemia es para elkarrekin podemos izquierda unida

al injusto modelo económico en el que está asentada nuestra sociedad

y nosotros un cambio en la distribución de la riqueza que se crea aquí en euskadi y la aplicación también de políticas que eviten

de nuevo la cuenta hemos escuchado que el virus no entiende de clases sociales que nos afecta a todas por igual no es cierto el impacto

recursos económicos y sobre todo las consecuencias sociales y económicas las está sufriendo la clase trabajadora de este país consecuencias de la pandemia pero consecuencias también de determinadas decisiones y actitudes políticas con las que se afronta la misma

en estos meses de pandemia despidos en empresas que han generado cuantiosos dividendos a sus accionistas y propietarios en los últimos años

de reducciones salariales mensajes de nuevo sobre la necesidad de arrimar el hombro a las y los empleados públicos algo que ya sabemos en que se traduce falta de profesionales en la atención o de profesionales suficientes en la atención primaria de nuestros centros de salud caos e improvisación ante el inicio en nuestro sistema educativo falta de negociación con los sindicatos y llamamientos casi exclusivos a la responsabilidad individual ante un problema colectivo

para elkarrekin podemos izquierda unida estos son los mimbres con los que se presenta la candidatura que hoy obtendrá la mayoría absoluta de este parlamento

no será con nuestro apoyo es cierto que ante la pandemia todos hablamos de la necesidad de acuerdos y colaboración el lehendakari que hoy se elige con nuestro rechazo

una oposición hueca no va a encontrar una oposición fundamentada en la confrontación porque sí nuestro grupo va a actuar

sobre cada política concreta serán sus contenidos los que marcarán nuestra posición de confrontación o de acuerdo hoy rechazamos su candidatura porque no compartimos

modelo que supone mayor gasto y peores condiciones laborales para las y los trabajadores un modelo de conciertos y adjudicaciones

que están en constante conflicto con las y los trabajadores por sus condiciones de trabajo no compartimos su modelo educativo que sitúa a euskadi como el territorio del estado y de toda europa que más porcentaje de dinero público destina a subvencionar la enseñanza y no compartimos un modelo basado en una fiscalidad injusta donde la principal carga impositiva sigue cayendo sobre la más que castigada clase trabajadora durante cuatro años

eso sí los únicos cambios que conocimos se pactaron con el partido popular ahora en dos mil veinte nos vuelven a decir que es pronto mientras tanto

las diferencias entre las rentas del capital y las rentas del trabajo

de la desigualdad que la pandemia solo puede agravar si no se cambian esas políticas por eso en elkarrekin podemos izquierda unida lo tenemos claro si no se cambia el modelo fiscal esa reconstrucción de la que hablamos hogeita hamarzintaren amaiera hogeita hamaikagarrena zintaren hasiera puede agravar si no se cambian esas políticas por eso en elkarrekin podemos izquierda unida lo tenemos claro si no se cambia el modelo fiscal esa reconstrucción de la que hablamos todas y todos la acabará pagando exclusivamente

como saben nuestra coalición se presentó a las elecciones con un mensaje

fundamentado en algo que dije aquí hace cuatro años no compartimos el modelo de país y las políticas del pnv y por eso planteábamos construir la alternativa desde la izquierda a esas políticas con un programa de mínimos y con la única opción aritmética posible en el parlamento al igual que hace cuatro años

sin tan siquiera esperar a los resultados electorales

revolucionaria por eso nosotros les décimos que ni nos arrepentimos de ese planteamiento ni vamos a renunciar a seguir intentando construir es alternativa

su oasis vasco hacía ya aguas antes de la pandemia

con la precariedad laboral con el clientelismo partidario y

hoy desgraciadamente y a golpe de coronavirus

que viven por debajo del umbral de la pobreza más las necesidades de recursos humanos y materiales para apoyar la salud el cuidado y la educación pública y más

y menos la inversión en cultura o en apoyo al sector primario gaur inoiz baino gehiago

jarri behar ditugula los gestos de solidaridad y de generosidad que la ciudadanía vasca ha demostrado durante la pandemia nos demuestran algo y es que la empatía la cooperación y el compromiso siguen estando vivos

de tantos años de bombardeo de dogmas neoliberales del

desde luego si la crisis sanitaria provocada por la covid diecinueve nos ha demostrado algo

batzuen eskubideak zapaltzea y tampoco vale seguir mirando para otro lado ante la precarización de las condiciones de trabajo

menos cuando a este sector privado le hemos dado la llave de la gestión de derechos fundamentales

o ante la grave situación que están pasando también las pymes o ante la juventud que ve cómo cada vez su acceso al mercado laboral cada vez más difícil su acceso al mercado

el problema el problema señor urkullu no es solo que las trabajadoras de residencias tengan unas condiciones de trabajo pésimas el problema es que la privatización de las residencias no puede ser la excusa para despreocuparnos del cuidado a nuestros mayores y para lavarnos las manos en garantizar unas condiciones de trabajo dignas a quienes los proporcionan honengatik

alde bozkatuko por eso y por otras razones creemos que este país necesita un cambio de rumbo pensamos que debe dejar de plegarse sumisamente los dictados

pensamos que este país necesita cambiar profundamente sus prioridades creemos que para cambiar las políticas económicas tenemos que cambiar también la cultura

y que se basa en subordinar la democracia al mercado los derechos humanos a la rentabilidad económica y sustituirla por una cultura económica

el enriquecimiento individualista e insolidario sino en el bien común y en los cuidados de la comunidad es decir en garantizar

eta solidarioa delako da son mérito de la sociedad vasca y no de sus gobernantes una sociedad vasca por cierto que es diversa

era una tierra que les ofrecía posibilidades de trabajo y de prosperidad prácticamente la mitad de la actual sociedad vasca procede de otros territorios y ahora

y de tránsito a pesar de esta europa fortaleza que está ahora de moda queremos seguir garantizando una acogida digna para toda persona que llegue a nuestra tierra no solo por ser solidaridad sino porque es de justicia porque primamos

y no solo somos cada vez menos oasis económico también somos cada vez menos oasis social y es cierto intentan siempre justificar sus políticas neoliberales con

pero por mucho que intente patrimonializarla la rgi existe gracias a la presión de la sociedad civil vasca y al acuerdo

que hubo en su día entre todas las fuerzas políticas representadas en este parlamento vasco es un logro colectivo

de nada en el ámbito económico y social tampoco somos ajenas a la desigualdad que el heteropatriarcado supone para la mitad de la población vasca para las mujeres

sexuales diversas nos afecta la brecha salarial al igual

de pobreza quince mujeres son agredidas en euskadi cada día por el mero hecho de ser mujeres y

de la ertzaintza según el propio informe de emakunde la igualdad en época de pandemia en dos mil diecinueve en nuestra comunidad autónoma tres mil noventa y ocho mujeres fueron agredidas por sus parejas

hombre de su entorno familiar lo sabemos porque así lo reconocen no solo organismos como emakunde sino también quienes trabajan desde el ámbito de la justicia que por cierto

del fenómeno porque el propio sistema judicial refuerza la violencia estructural que termina materializando en agresiones asesinatos machistas toda evidencia previa del trabajo sobre la violencia machista en contextos de crisis como la ha supuesto una alerta de que la situación de las mujeres se ve agravada

y la necesidad de puesta en marcha de reformas estructurales y sin embargo vamos tarde podíamos haber contado ya con herramientas eficaces en la lucha contra la violencia machista pero dejaron pasar la oportunidad en la legislatura pasada de adaptar la ley de igualdad a los deberes de protección de las víctimas que el convenio de estambul

nos preocupa la lgtbifobia que siga estando presente en nuestras calles y en nuestras instituciones y que no sea encarada con un despliegue de política y recursos eficaces

a sentir y a amar como quieran sí han sido políticas partidistas del pnv

y en estas desgraciadamente no encabezamos los ranking en primer lugar porque en estas cuestiones

los países más avanzados del norte de europa demuestran que la desigualdad solo se combate con impuestos suficientes y progresivos y con la inversión social fuerte y ninguna de estas cosas las han hecho los gobiernos anteriores por eso la desigualdad y el porcentaje de personas en riesgo de precariedad día a día bajo los gobiernos vascos

a nosotras tome como referencia la última encuesta de pobreza y desigualdad social publicada el pasado junio de dos mil diecinueve de su propio departamento de empleo que reflejaba el incremento del riesgo de la pobreza

que señalaba el aumento de la pobreza en las familias y del fallo del sistema de protección social para atender a todas aquellas personas que lo necesitan y todo esto eran ya datos anteriores al impacto del covid diecinueve en nuestra comunidad autónoma eta besterik gabe onar ezazue

solo aprovechando los recursos de una comunidad sus infraestructuras su seguridad su sistema educativo su sistema sanitario alguien puede hacerse rico y existe una importante deuda de las élites respecto a esta sociedad en cuyo seno han podido enriquecerse

sin embargo ustedes insisten en que los poderosos no paguen por sus fortunas o que paguen menos que en otros territorios por los beneficios empresariales y que obtengan exenciones a los que

lo mismo que con la presión fiscal sucede con la inversión social que en algunos sectores también es inferior en euskadi al de otras comunidades autónomas de que tienen en ocasiones menos recursos que la nuestra creemos que no podemos salir de esta experiencia que nos ha brindado

ha visibilizado las costuras endebles de nuestro sistema que nos ha mostrado la fragilidad y la insostenibilidad

a la vida no podemos salir sin aprendizajes con las mismas fórmulas que nos han llevado hasta aquí

para con todas las personas que han sufrido en esta pandemia porque es hora de que la política vuelva a ser un instrumento eficaz real

atravesado o estamos atravesando una crisis económica y social fruto de la pandemia sino que nos enfrentamos también a una crisis más profunda

parece que no estamos dándole importancia que no la queremos ver que no existe y que sin embargo está ahí y es la desafección

siente por las instituciones como herramienta útil de cambio

individualmente y como mejor podamos me gustaría recordar que

se ha conformado es solo el reflejo de la voz de los proyectos políticos que respaldan apenas un cincuenta por ciento de nuestra sociedad

como su casa que se sienta participe y tenga voz propia en las decisiones de esta cámara

levantarnos contra esa sensación de que las cosas no pueden cambiar queremos recordar que

cooperando tejiendo redes cuidándonos es como se afrontan los retos

en el ejercicio de nuestra soberanía de nuestro autogobierno para afrontar estos retos

para usarlo pero no como veto para frenar cambios estructurales que sí necesitamos jendearen subiranotasuna nahi dugu

en el centro y vamos a trabajar vamos a trabajar para que el derecho a recibir cuidados no se traduzca

sino como una obligación de este gobierno de todas las instituciones públicas de garantizarlos para que como sociedad asumamos la corresponsabilidad de los mismos

abordar la reorganización social de los cuidados para avanzar en igualdad real para garantizar la sostenibilidad de la vida y no caben más excusas para acometer esta tarea en los últimos años las trabajadoras de las residencias las limpiadoras de instituciones públicas así como las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio son

pero que no solo reclaman unas condiciones dignas para su trabajo también sino que lo hacen también desde la conciencia de que los cuidados que prestan

a las personas que dependen de ellas en los últimos años en especial durante esta pandemia

un régimen de trabajo que se caracteriza por la explotación laboral que sufren y que les deja al margen de cualquier protección social o económica

vamos a trabajar por lo común y por los servicios públicos de calidad como la educación la reapertura del curso nos pone

ante el más general del modelo educativo y de cuidados y es que creemos que solo una educación pública de calidad garantiza la igualdad de oportunidades

por ejemplo como se hace en finlandia que se considera el país con el sistema educativo más igualitario y eficiente del mundo

es la consideración de que el sistema educativo es un instrumento para la igualdad de oportunidades ustedes han promovido una política contraria

en el que una parte importantísima de los recursos públicos acaban en instituciones privadas que no tienen la igualdad de oportunidades como prioridad y que reproducen además la desigualdad social en la pasada legislatura usted tuvo la posibilidad de corregir el sesgo fue la propia ciudadanía la que se lo pidió a través de una iniciativa legislativa popular que fue promovida por eraikiz

inclusiva y se negaron siquiera a darle trámite y es porque no aquí no entendemos la escuela como se entiende en finlandia ustedes la entienden como un instrumento al servicio de las necesidades del mercado y no

igualitaria nuestra labor fundamental

ahora algo que es solamente un sistema educativo público inclusivo laico y gratuito

sino que también tenemos la oportunidad de aprender a cuidarnos trabajando juntas y juntos desde la empatía y reconfortarnos hoy mismo al hilo de esta cuestión se ha dado a conocer la convocatoria de la huelga educativa convocada por los sindicatos vascos para el quince de septiembre reclamando

y consensuada y desde aquí me gustaría demostrar nuestro apoyo a esta reivindicación y nuestra voluntad de trabajar por garantizar la vuelta al cole y el derecho a la educación de los niños y niñas queremos trabajar también para hacer real el derecho a la vivienda hace falta intervenir sobre el mercado de la vivienda en esta comunidad en la que en los últimos tres años

la ley vasca de vivienda reconoce el derecho subjetivo a ocupar legalmente una vivienda digna pero se ha garantizado de forma efectiva hoy mientras aquí deliberamos sobre la formación del próximo ejecutivo vasco victoria

de su deshaucio seis días y seis noches

en el que esa promesa institucional de una vivienda protegida se convierta en una pesadilla

de su hogar cuyo suelo pertenece al gobierno vasco qué ha pasado qué ha pasado para que la vivienda protegida que buscaba garantizar un hogar digno para las personas más vulnerables de nuestra sociedad

de entrada al capital especulativo internacional

queremos trabajar también para que la protección del medio ambiente no se quede en una mera declaración de intenciones

y limpio que cubran las necesidades de todas las ciudadanas no de unas pocas que pueden permitirse por dinero y ubicación viajar en un tren de lujo que además

degradación ambiental sin retorno nosotros lucharemos también por una producción de energía limpia

de transición ecológica lucharemos también para que todas las ciudadanas

impulsando la democratización del sistema energético a través del autoconsumo de la generación compartida y de las cooperativas energéticas y voy terminando

nuestro grupo parlamentario se abstendrá en las propuestas de designación del lehendakari que se presenta

de gobierno que no compartimos y su pacto con el psoe además solo asegura más de lo mismo nuestra intervención en el pleno de investidura de hace cuatro años en este sentido es hoy de rabiosa actualidad porque con ello

este pacto solo sirve para que un partido que se llama de izquierdas se diluya en una

sea viable no apoyaremos tampoco la candidatura de maddalen iriarte porque no tiene opciones de prosperar y porque no puede tenerlas además desde el momento en el que no integra a las

siempre hemos apostado por la suma de las fuerzas progresistas que en euskadi existimos para generar el impulso

en campaña y lo volvemos a repetir en todo caso en todo caso nuestra oposición va a ser constructiva creemos que el momento tan grave que está atravesando en nuestra sociedad con esta pandemia nos exige

extra de responsabilidad vamos a arrimar el hombro y vamos a seguir trabajando con lealtad y con sentido de la responsabilidad como hacemos en todas las instituciones en las que estamos desde nuestra postura crítica con sus políticas vamos a seguir trayendo a este parlamento nuestras propuestas y también aquellas de la sociedad civil que promueven una sociedad más libre y menos desigual e insostenible

y que en nuestra opinión vayan en sentido contrario indar politiko guztiekin hitz egiteko asmoa dugu horretarako eta eskua

aquí le traigo el papelín por si usted considera que esto es un papelín de noventa y siete páginas que esté tranquila la presidenta

del mismo pero sobre todo quería decirles que todas las sesiones de investidura son distintas todas son especiales porque marcan los proyectos la guía de actuación desde la que se quiere dirigir el país y esta cámara ha vivido doce experiencias distintas en contextos muy duros especialmente las nueve investiduras que estuvieron marcadas por el terrorismo

directa a una parte de la sociedad y a sus representantes y logramos vencer esa amenaza precisamente porque este parlamento nunca renunció a seguir haciendo política porque hacer política sirvió para levantar los servicios públicos

la red de protección social para progresar todos juntos nuestro recuerdo siempre a quienes lo hicieron posible aunque para ello se jugaran la vida

siempre sortear todas las crisis económicas y sociales de los últimos cuarenta años y ahora nos enfrentamos a otra crisis extraordinariamente dura inédita dolorosa por eso los socialistas no nos vamos a distraer euskadi no se lo puede permitir se lo debemos

que han fallecido en esta crisis sanitaria a los profesionales sanitarios y científicos a los docentes a los hosteleros y a los comerciantes

en la logística y el transporte a quienes han perdido su empleo o temen hacerlo a los emprendedores a los jóvenes que buscan su primera oportunidad y a los mayores

a ellas y a ellos nos dirigimos cuando sumamos por una causa común somos mucho más fuertes así salimos de la primera prueba que nos puso la pandemia durante dos meses y así es como vamos a conseguirlo ahora para reconstruir social y económicamente

todo ese potencial que tenemos como sociedad necesita una respuesta institucional a la altura por todo eso necesitamos que todos los esfuerzos de quienes nos sentamos aquí y todos los del próximo gobierno vasco se centren en las soluciones porque lo que está en juego es que salgamos de esta

y que lo hagamos todos esta es la realidad que nos tiene que ocupar en esta sesión la de una pandemia a la que ninguno de los que estamos aquí nos hemos enfrentado nunca antes y es esto lo que nos ha guiado a los socialistas en los compromisos adquiridos en la campaña electoral

en esta legislatura el compromiso que hoy ratificamos una hoja de ruta clara para un gobierno fuerte con soluciones que no dejen a nadie

con el apoyo socialista en primera votación sin tener que esperar más es la primera vez que ocurre esto en una década

los socialistas nos atrevemos a dar un paso adelante hoy volvemos a pensar en la ciudadanía por encima de cualquier otra consideración para ofrecer a euskadi un gobierno sólido en el que pueda confiar de nuevo por encima de cualquier otro cálculo nos comprometemos no queremos quedarnos en señalar con el dedo lo que falta por hacer los señalamos decimos cómo creemos que hay que actuar y nos comprometemos a resolverlo lo hacemos

la mayor etapa de sosiego de su historia porque se podrán hacer todos los análisis que se quieran sobre la legislatura pasada pero lo honesto por parte de todos es reconocer que la apuesta por reencontrarnos con el diferente para caminar juntos ha sido decisiva para afrontar la crisis que vivimos con bases

lo que ha funcionado hay que preservarlo y hoy con nuestro voto nos comprometemos a blindar esa estabilidad y pluralidad en un momento crucial

esta es la certeza que ofrecemos a los vascos esta es la base sobre la que nos proponemos ampliar los espacios de encuentro y los consensos una base sólida para un gobierno fuerte con una marcada impronta

eso es lo que está recogido en el acuerdo de gobernabilidad que ha explicado el candidato a lehendakari esta mañana no es una recomposición de otros acuerdos previos no es una actualización del anterior es un acuerdo rehecho de abajo arriba acorde con la crisis y acorde también con la fuerza añadida que aportamos

la que garantiza un gobierno fuerte porque euskadi no merece un gobierno débil que juegue cada semana con las urgencias de la ciudadanía ni con las reformas necesarias hemos sido claros en todo momento nuestros escaños no iban a servir para jugar a los dados

iban a servir para reconstruir euskadi y prepararla para el futuro incluso desde la oposición nos habríamos implicado en esa tarea como ya lo hemos hecho en el pasado pero hemos compartido con el partido nacionalista vasco una reflexión integral de la situación

los socialistas nos implicamos en una respuesta histórica para un momento histórico que nos exige también una responsabilidad histórica lo dejamos claro incluso durante la campaña electoral nosotros no pedimos el voto para poner zancadillas a nadie

desde el lugar que nos corresponda y los votos que nos han dado los ciudadanos a los socialistas permiten hoy el gobierno más fuerte de los últimos veintidós años

los deberes pendientes de la legislatura anterior y seguir adelante teníamos que poner en hora los relojes de todas las instituciones porque todas toman

para el futuro ayuntamientos diputaciones gobierno vasco y gobierno de españa y este es también un factor que hace diferente este acuerdo al de hace cuatro años aparte de la emergencia sanitaria y social que estamos viviendo porque hace cuatro años los socialistas nos comprometimos con la gobernabilidad de euskadi

es que además lo hicimos cuando ambos partidos teníamos una posición muy diferente con respecto a las decisiones del gobierno de españa que entonces presidía el señor rajoy

la unidad de acción de nuestro gobierno porque nuestro acuerdo para euskadi tenía bien marcados los objetivos que incluimos los socialistas en clave de progreso e igualdad

el entendimiento institucional gobernara quien gobernara en esta ocasión contamos con una ventaja añadida que los dos partidos que vamos a compartir gobierno en euskadi

para el conjunto del país en este sentido los socialistas nos sentimos doblemente responsables porque somos los dos gobiernos el de españa y el de euskadi y nos sentamos a los dos lados de la mesa pero no solo en esos dos gobiernos

de los municipales de las diputaciones y de la comisión europea y es así como creemos que podemos hacer útiles las políticas de izquierdas con el alineamiento de los gobiernos caminando con un mismo rumbo y ese es otro de los motivos

implicamos nuevamente en cogobernar euskadi una colaboración

porque nadie tiene la receta perfecta y completa la verdad absoluta ni la varita mágica con la que salir de esta no la tenemos nadie de los que estamos aquí ni nadie fuera de aquí creo que es el principio de realidad y de humildad con el que todas las parlamentarias y parlamentarios

tenemos propuestas tenemos ideas tenemos distintos ritmos para ponerlas en marcha

los apoyos necesarios no solo para que salgan adelante sino para que sean sólidas para que tengan un recorrido fiable en algunas no nos pondremos de acuerdo eso vamos a admitirlo desde el principio pero este es mi tercer compromiso aquí junto con el voto al candidato

y el blindaje de la estabilidad los socialistas buscaremos encontrarnos con quienes quieran una salida justa que

para esos objetivos no sobran ideas ni aportaciones de nadie

ni en una mayoría absoluta ni en esta legislatura este plan está pensado para una generación para actuar en lo urgente y para no demorar lo necesario para garantizar la salud de toda la ciudadanía vasca para reactivar la economía para recuperar los niveles previos a la pandemia

a los nuevos retos y necesidades para no dejar a nadie atrás en ninguno de los parámetros que definen a una sociedad cohesionada

y tenemos que acertar tenemos que centrarnos en acertar tenemos que volcarnos en dialogar y acordar porque si no acertamos estaremos condenando el futuro si no acertamos a dar las soluciones urgentes si no acertamos a enfocar las reformas necesarias si no acertamos en buscar todos los que estamos aquí el diálogo sincero

cuentas por eso hemos querido que lo primero sea fijar las bases para la reconstrucción social y económica de euskadi de acertar en las prioridades

es lo que ocupa la primera parte del acuerdo un plan compartido de reconstrucción del conjunto del país que requiere un esfuerzo de garantía de la salud protección de rentas

y décimos con claridad que nuestra propuesta de gobierno no es para poner parches ni para dejarnos arrastrar por la inercia atendemos las urgencias

para esta nueva era gestionar el presente y preparar el futuro como nos enseñó el primer lehendakari

ramón rubial sin parches pero sin empezar de cero como si no hubiera nada hecho tenemos mucho adelantado en este parlamento

borrón y cuenta nueva horrexegatik gure

y para que sea la verdadera antena que detecte cualquier nuevo brote de epidemias porque el sistema público tiene que garantizar la salud de los dos millónes de vascos a la vez pero no puede ni debe estar preparada para que los dos millónes de vascos estemos a la vez en los hospitales

es reforzar los centros de atención primaria con personal estable y bien formado principalmente de enfermería y reforzarla con recursos materiales suficientes para detectar cualquier alerta que permita una derivación adecuada

los medios materiales y para garantizar ese material necesitamos a nuestro tejido empresarial y al sistema científico y tecnológico y otra cuestión estratégica

la atención sanitaria a la tecnología a nuestro alcance y a la inteligencia artificial si lo hacemos bien

mucha presión del sistema de consultas externas y de la atención primaria la telemedicina las consultas médicas telefónicas y la receta electrónica que pusimos en marcha

nos abren inmensas oportunidades los fondos europeos son una oportunidad para enganchar a euskadi a ese reto en la innovación de la sanidad y es también el momento de hacer de euskadi un espacio sociosanitario completo desde la cooperación

integral que conecte todos los recursos de todas las instituciones es la vía para garantizar que los más vulnerables especialmente los mayores no queden desatendidos que puedan mantener su autonomía que se sienten seguros vivan en una residencia o vivan

vamos a revisar todo lo que haya que revisar para garantizar la financiación de los servicios sociales y para mejorar la atención en residencias e impulsaremos el fondo de cohesión

la tecnología y la creación de puestos de trabajo en cuidados también los recursos europeos nos ofrecen ahora la oportunidad para desplegarlo no podemos perder

bide hori jarraitu behar dugu en la emergencia hemos sabido sacar fruto a una herramienta de nuestra legislación laboral

un ingente esfuerzo del gobierno de españa que hemos acompañado desde euskadi con el complemento a los ingresos más bajos muchas de nuestras empresas y sus trabajadores los siguen necesitando

que si superan el bache de la pandemia van a seguir siendo proyectos de éxito y van a seguir creando empleo vamos a necesitar la complicidad del gobierno de españa para que en esos casos

y vamos a hacerlo de la mano de los propios agentes sociales en la mesa de diálogo social que es otro de los grandes aciertos y los grandes valores que vamos a reforzar porque

de los agentes sociales en los programas de empleo los socialistas creemos en el diálogo social y lo recuperamos como instrumento de concertación hace una década pero ahora esa mesa es un foro permanente de participación real en las políticas públicas para atajar la brecha salarial para impulsar la formación profesional o mejorar la salud laboral y en esa mesa es donde queremos definir el gran acuerdo por el empleo y la reactivación económica para fijar las políticas sociolaborales que nos hagan superar esta crisis es un claro compromiso que adquirimos los socialistas y que vamos a mantener necesitamos a los empresarios y a los sindicatos

y a todos les vamos a volver a pedir que se sienten a esa mesa la recuperación del empleo necesita de esa concertación y fijar la mirada en los más vulnerables los desempleados y trabajadores de más de cuarenta y cinco años que necesitan planes personalizados los jóvenes que necesitan un plan específico las mujeres las grandes paganas de las crisis y que tienen que engancharse

más cualificados pero esas oportunidades de empleo solo llegarán si somos capaces de establecer una estrategia integral en todo nuestro sistema productivo de todos nuestros sectores

hostelería y turismo son más que una fuente de empleo y riqueza son quienes dan cohesión y vida a nuestras ciudades y pueblos por eso nos comprometemos a intensificar

no son compartimentos estancos de cada partido es un compromiso de país

compartida así que los proyectos estratégicos los definiremos con todas las ideas y recursos protegiendo los derechos laborales y el medio ambiente y los vamos a colgar de la inteligencia artificial porque ya compartimos

y algunas empresas los gestionan con gran eficacia comercial queremos que sean las administraciones públicas quienes aprovechen esos datos para el progreso y la protección social

para apoyar los proyectos generadores de empleo y competitividad porque estamos inmersos en una profunda transformación que la pandemia no ha hecho más que acelerar pero un salto adelante en tecnología y en modernización no puede ser un salto atrás en derechos

en la brecha salarial que padecen las mujeres y en la lucha contra el fraude laboral y no vamos a dar un paso atrás es verdad que necesitamos un nuevo marco de relaciones laborales y ese marco tiene que llegar con un amplio acuerdo entre agentes sociales y distintos partidos en el congreso

la nueva economía pero mientras tanto desde aquí vamos a reforzar la inspección de trabajo para garantizar el correcto cumplimiento de las jornadas laborales y perseguir el fraude y salud para todos empleo de calidad y no dejar a nadie atrás

tercer gran eje para construir euskadi vamos a reformar la ley de garantía de ingresos para llegar a quien lo necesite pero sobre todo para que cada vez la necesite

y conseguir ingresos dignos partimos del mejor sistema de protección que existe en españa ahora tenemos que integrar la gestión del ingreso mínimo vital

de la reforma siguen siendo llegar con más intensidad donde hay menores en riesgo o mayores con pensiones insuficientes mejorar la gestión de los trámites

dejemos las guerras de cuantías y las visiones caritativas hablamos de garantizar un derecho básico a ingresos suficientes no empecemos de cero en esto tampoco

indartu kalteberatasun bereziko egoeran dauden ikasleentzako también tenemos un reto pendiente el despliegue definitivo del derecho subjetivo a la vivienda contamos con la ley más progresista de españa y nos comprometemos a culminarla

de los jóvenes pero vamos a prestar atención a las condiciones en las que viven nuestros mayores porque necesitan garantías

hay que facilitar la adaptación de sus hogares incluso facilitarles otros alternativos pero queremos promover fórmulas de convivencia intergeneracional que no haya guetos

que convivan en los mismos edificios y barrios necesitaremos para eso la colaboración plena de los ayuntamientos y de la iniciativa privada pero de momento contamos con una gran herramienta

esa es la guía del futuro para una regeneración en términos sostenibles y de convivencia y en la agenda de este gobierno habrá de nuevo un principio transversal a todas las políticas la igualdad plena de la mujer ya estaba en todas las actuaciones de la anterior legislatura

allí compartimos que un empleo digno y cualificado es una herramienta más para que muchas mujeres puedan soltarse del lastre de la dependencia pero tenemos una razón añadida

de los discursos que cuestionan la igualdad los que alimentan que la mitad de la población siga siendo ciudadanía de segunda cuando no dirá directamente explotada y agredida este parlamento se ha pronunciado en el pasado de forma unánime en defensa de unos principios compartidos pero tenemos que ser agentes proactivos que combatan el discurso de la discriminación y que protejan a quienes tienen tantas razones para sentirse inseguras por eso recuperamos la reforma de la ley de igualdad que trabajamos

vamos a poner las cosas más fáciles a las mujeres y mucho más complicadas a los agresores y esperamos que en esta labor con la inmensa mayoría de esta cámara y vamos a poner las cosas fáciles al futuro la transición ecológica es la herencia que vamos a dejar todos los que estamos aquí a nuestros hijos y no es solo cuestión de medio ambiente porque para los socialistas las políticas de medio ambiente van unidas a las económicas y a las de empleo son también una política de igualdad porque quienes se queden descolgados tendrán menos oportunidades así que no es una política parcelada

aprobamos la ley de sostenibilidad energética declaramos la emergencia climática establecimos una estrategia de economía circular

europeo ahora nos toca culminar la revolución normativa para que el compromiso medioambiental sea un activo en nuestros hogares nuestro consumo en el empleo y también en la movilidad por eso es un compromiso irrenunciable del próximo gobierno y sí

exigente y tendremos menos recursos de los previstos pero los socialistas tenemos claro que esta no va a ser la excusa para que la salida de la crisis no sea justa tenemos que rescatar a las personas y tenemos que apoyar a todos los emprendedores y empresas a quienes

bien y generando empleo contamos con varias cosas a favor una gestión rigurosa en todas nuestras instituciones que deberán ordenar todos sus recursos disponibles

unos fondos extraordinarios del gobierno de españa y de la unión europea para los gastos realizados durante la pandemia una capacidad de endeudamiento que debe cerrarse en una próxima comisión

que responde a nuestros retos y a las de nuestras empresas y un margen en la lucha contra el fraude fiscal

hablaremos de la fiscalidad como herramienta para reforzar los servicios públicos y para apoyar a la economía generadora de empleo una reflexión sobre la necesaria

en términos de mayor progresividad y que permita adaptarse a la economía y a los retos emergentes así que para los ingresos que necesitamos va a ser de nuevo necesario

reiteraré la posición socialista si renovamos ese pacto que sea para que quepamos más

como han hecho todas las demás comunidades autónomas que sea para mejorar la vida de la ciudadanía y reforzar la cohesión social si queremos que eso sea útil tiene que ser viable tiene que respetar el ordenamiento jurídico ese es el sentido que tiene el autogobierno un pacto de convivencia que garantice

moderna plural cohesionada e igualitaria un pacto en una españa diversa y en un proyecto de cooperación con las demás comunidades autónomas y con europa

pendientes he citado muchos de los retos que tenemos como sociedad la mayoría los compartimos con todas las sociedades de nuestro entorno pero los vascos tenemos un reto

que todos sin excepción asumamos que el terrorismo fue profundamente injusto que matar secuestrar extorsionar amenazar perseguir o torturar

un horror y un error que jamás debió de ocurrir el gobierno vasco del que vamos a participar se sustenta en ese principio ético irrenunciable

que se haya producido en el pasado o que se produzca en el presente que nunca hay ni ha habido una razón política ni de estado que pueda despojar la dignidad humana

y que todas las víctimas merecen memoria justicia y reparación tenemos muchas deudas con las víctimas tan plurales como lo es la propia sociedad vasca

con la reparación de todas ellas lo sabemos bien especialmente algunos en esta cámara también nosotros los socialistas somos víctimas pero no nos vamos a arrogar nunca su representación y es lo que pedimos también al resto de grupos cada víctima tiene su propia voz y tiene derecho a ser escuchada

para que no haya una rendija por la que se cuele una sola justificación del daño causado sabemos que las heridas no se cierran bien y no se curan nunca hoy vemos todavía el desprecio con el que se trata a quienes sufrieron de forma injusta la represión

durante la dictadura también queda reconocer y reparar a esas víctimas adquirimos ese compromiso con ellas la pasada legislatura y este gobierno presentará

de memoria histórica una ley que les devuelva la dignidad que quisieron robarles en el pasado y que algunos se empeñan en robarles en el presente porque

y compañeros parlamentarios tenemos que acabar definitivamente con la política de las trincheras yo en esta cámara no veo enemigos veo rivales políticos veo a personas que representan diferentes ideas

y hay ideas y proyectos que los socialistas no vamos a compartir nunca todo sectarismo toda intención excluyente todo lo que divida estará fuera

que podemos encontrarnos en muchas cosas más allá

pero mis enemigos los enemigos de los socialistas son la enfermedad

la desigualdad y el sectarismo eso sí que lo vamos a combatir y este parlamento como todos los anteriores no es más que un reflejo de la pluralidad de esa que tanto nos costó hacer valer y debemos tener la capacidad de gestionar

lo vamos a hacer en un gobierno plural para una euskadi plural esa es la forma de gobernar para todos de hacer política para todos para quienes nos votan a unos y para quienes votan a otros por eso invito al acuerdo sincero a todos vamos a contar con un gobierno de mayoría absoluta sí pero no va a haber rodillo y que nadie busque esa excusa

quienes en la pasada legislatura ante un gobierno en minoría no supieron influir en ninguna de sus políticas y para cuando se quiso reaccionar el calendario electoral marcó

ahora tenemos un horizonte electoral despejado no hay cita electoral en los próximos tres años invito a todos los grupos de esta cámara a aprovechar este tiempo

es tiempo de colaborar hoy se nos ha presentado una propuesta abierta pero con un objetivo claro la reconstrucción social y económica de euskadi desde criterios de progreso de igualdad de justicia social y de pluralidad de eso queremos ser corresponsables los socialistas vascos y por eso vamos a formar parte de un gobierno

tiene una mano tendida para construir una euskadi mejor la pandemia

mucho no hay todavía vacuna para atajarla pero sí tenemos una vacuna para garantizar la salud

y esa vacuna es la política con mayúsculas el mejor remedio para el rescate social y la reconstrucción de este país así pues les invito a que esta legislatura sea una legislatura provechosa porque la ciudadanía vasca

gure seme alaben irakasleen pandemiako bizipenak la vivencia de miles de trabajadores y trabajadoras temporales que de la noche a la mañana se han encontrado sin trabajo

la de personas autónomas que se vieron obligadas a depender de una página web que se colgaba en el primer minuto para percibir una ayuda imprescindible para seguir adelante

la de las mujeres precarias las empleadas del hogar muchas de las cuales se han visto en la calle

había sido incapaz de predecir su futuro de poder perfilarlo con cierta claridad y por ello necesitan recibir respuestas firmes desde las instituciones necesitan certezas del nuevo gobierno que se va a conformar y mucho cuidado porque en ausencia de respuestas claras ante la ausencia

lo digo porque parece que aquí se quiere instalar la idea de que todo iba bien hasta que llegó la covid diecinueve que teníamos un gobierno fuerte que estaba cumpliendo sus compromisos

baina covida heldu da eta hortik aurrerakoak se quiere instaurar la doctrina del paréntesis todo esto será duro será largo pero todo pasará y volveremos a estar como antes

que cualquier tiempo pasado fue anterior pero nada más que eso

su balance señor urkullu es el de un gobierno sin ambición en materia de empleo que relativiza

salarios estancados hasta que la conflictividad laboral arranca ligeras mejoras un gobierno alineado sistemáticamente con la patronal en todos los conflictos laborales usted ha llegado a ejercer prácticamente de portavoz de la patronal en conflictos

que en dos mil ocho y el peso del sector en el producto interior bruto estancado desde dos mil diez

por debajo del dos por ciento del producto interior bruto tan cerca de españa y cada vez más lejos de europa

ya estamos en la tercera división la falta de perspectiva la planificación y de liderazgo nos lleva a ser la sociedad más envejecida de europa con todo lo que esto supone dónde quedó señor urkullu el gran pacto

una política de vivienda residual y decreciente que nos deja alquileres desatados en máximos históricos

la vivienda es el principal factor de exclusión en esta comunidad autónoma señor urkullu

entre los cinco primeros puestos éramos los octavos cuando usted fue investido

y eso que usted nos ha dicho que hoy el nuestro es un modelo de desarrollo sostenible consolidado

la pandemia ha dejado en evidencia todas las carencias del sistema ustedes nos han mostrado no han mostrado voluntad alguna para tomar las riendas de una nueva institucionalización que responda a las necesidades de cuidados que tiene nuestra sociedad

su aportación ha sido la de abdicar en sus funciones

eta pandemiaren kudeaketaz ere hitz egin dezakegu y les voy a hacer una entresaca de las perlas porque hoy se ha hablado mucho ello urkullu decreta la emergencia sanitaria el viernes trece de marzo

lo que nos plantea no activa ninguna de las medidas contempladas en ella ha decretado el cierre de la hostelería y ya se le habían adelantado comercios hostelerías sidrerías urkullu afirma que descarta el confinamiento pedro sánchez lo declara dos días después

era un foro asambleario que no existe en ningún lugar y que paralizaría la toma de decisiones las mascarillas no eran necesarias según murga si pedro sánchez las llevaba sería

porque podíamos hablar también del ambientazo y la apertura de la muga de cantabria

si la comunidad autónoma vasca fuera un estado independiente seríamos el tercer país del mundo en el ranking de fallecimientos por habitante con setecientos veintiuno decesos por millón de habitante solo por detrás de bélgica y perú

no es la valoración de la gestión que hace euskal herria bildu se lo han dicho todos los sindicatos de la sanidad todos los sindicatos de la enseñanza se lo han dicho

que se dirige a los familiares de sus alumnos diciéndoles que los han dejado solos ulergaitza da gobernu honen negaziorako tendentzia paralisia

nos hablaba usted de realismo señor urkullu pues no es nada realista

en la gestión de esta pandemia ni en la anterior haya sido colaborativo

informar no es participar no es compartir no es colaborar no es

el liderazgo no debe ser el resultado de un mando unilateral o vertical

frente a los retos a los que nos enfrentamos nada de eso en su práctica cotidiana

ustedes no han sido capaces ni de hablar con sus socios de gobierno y han tenido que resolver sus discrepancias nos lo decía la señora

ha mencionado también la búsqueda de chivos expiatorios que no se buscaran chivos expiatorios hombre ba gobernu hau txapelduna da

es un gobierno que ha fracasado en tiempos de crisis que no ha aprovechado el viento a favor y ha fracasado en tiempos de bonanza y que desde luego ha fracasado en la gestión de esta pandemia

ni un modelo de gobernanza colaborativo ese es el principio de realidad

urkullu jauna y hoy hemos conocido su acuerdo de gobierno lo hemos conocido hoy un acuerdo tan firme que ustedes tenían miedo de que pudiera destrozarse en cuarenta y ocho horas lo han querido guardar con celo un acuerdo

a las enmiendas que nos suelen presentar los grupos que sostienen al gobierno de continuar haciendo lo de siempre

aquello que no han cumplido porque eso lo han borrado de los acuerdos

ba bada marka y principio de realidad rigor

usted no nos ha dicho una palabra sobre cómo pretende financiar todo

ni ha querido compartir con nosotras ninguno de los proyectos que usted haya presentado

en esta cámara hay ejemplos de acuerdos amplios y muy importantes por ejemplo el de la ley de sostenibilidad energética un acuerdo muy amplio

nuestro escepticismo señor urkullu con respecto a lo que nos ofrece pues se basa en el principio de realismo y de credibilidad

nos pedía también responsabilidad y crítica constructiva nuestra actitud propositiva y constructiva se ha demostrado jueves tras jueves en este parlamento y fuera de él

en todo caso tengan claro que euskal herria bildu no va a renunciar a una de las principales funciones que se asignan a la oposición en una democracia saludable

no se trata de erosionar al gobierno o de generar bloques se trata de que cada uno desempeñe su función con responsabilidad y si a nosotras nos toca estar en la oposición cumpliremos con nuestra función no lo duden actuaremos con altura de miras con responsabilidad y con lealtad

a nuestro pueblo responsabilidad toda pero cheques en blanco

pero resulta que sí que sí se ha dado un acercamiento un acercamiento del pnv a los postulados del partido socialista de euskadi

el derecho a decidir la nación foral la relación confederal con el estado ondorioa da gobernu honek ez duela

tresna gureganatzeko proiekturik ez du gobernu honek esta es la historia de una renuncia nacional

bagaje dos legislaturas prometiendo consultas que no se materializan llueve sobre mojado

acerca del compromiso con el derecho a decidir donde el partido nacionalista vasco escribió una página bochornosa la página de la renuncia nacional la renuncia al nuevo

autónoma vasca su partido ha decidido ceder la llave para decidir los límites del autogobierno al partido socialista de euskadi

ya lo señalábamos en campaña estamos asistiendo a la conformación de un gobierno de contención el partido socialista de euskadi contiene al partido nacionalista

y el partido nacionalista vasco contiene al partido socialista de hacer políticas progresistas finean

hau ez da merezi dugun herria necesitamos un nuevo gobierno una nueva forma de hacer política y una nueva gobernanza

a las situaciones que estamos viviendo y a los retos complejos a los que nos enfrentamos usted no puede hacerlo señor urkullu conocemos su modelo de gobernanza

y no tiene ni la visión ni la ambición para asumir el liderazgo político que se requiere para poner en marcha las políticas que requiere esta parte del país es una cuestión de credibilidad esto solo lo puede hacer euskal herria bildu esto solo lo puede hacer el proyecto

y también la menciono yo para terminar mi intervención porque no estamos aquí para aceptar lo que no podemos cambiar sino para cambiar

bueno es que herri honen bueno askotan esaten dute ez zuen buruzagiak es que el pnv narcotiza la sociedad

pero la tesis de la vanguardia ez abanguardiak zer esaten du

imagina volver a empezar un país en marcha digo yo imagina volver a empezar de qué viaje hemos venido o quién

esaten da este modelo de confinamiento esaten da ha sido diseñado en función de los intereses del capital y de las grandes empresas y como citáis aquí al capital y a las yo no sé si hay algún accionista aquí pues que lo sepamos las personas y la salud no están en el centro de las decisiones que se están adoptando esto nos ha llevado a sufrir un duro confinamiento el capital el capital

vamos a disputar el poder al capital en todos los frentes en las empresas en la calle y lo vamos a hacer también en las instituciones luego nosotros

y vienen venís a disputar el poder en las instituciones luego

duda despejada se trata simple y llanamente de lucha de poder ese es el planteamiento que se está haciendo quien piensa y opera

en esas claves yo no sé en qué mundo o en qué

tierra vive pero conjugar estos planteamientos y estos posicionamientos con esta disposición suave

no son compatibles son simples señuelos los planteamientos que se están haciendo de colaboración

utilizar como se ha utilizado la alarma sanitaria la desgracia o la calamidad también en zaldibar para

dicen que sirve para crear las condiciones objetivas y subjetivas que permitan

al triunfo revolucionario sino desterrar o sacar

porque retrasar la activación económica posconfinamiento añorando

que estos criterios que todavía figuran en algunos manuales afortunadamente están caducados y prescritos pero

las reformas necesarias para adecuar la estructura del estado

acordando en su caso las modificaciones legales necesarias a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo estatuto de la comunidad autónoma del país vasco atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia

parlamentu honetan eta hori esplikatuta ba agian gauzak argiago geratuko zaizkigu y el pacto con el pse es más de lo mismo

eta orain diozu gobernu indartsu bat izango dela y que es hora de arremangarse pues

yo creo que estar en política y entrar en política sabe usted muy bien que

de este país las que trabajan en diferentes aspectos están todas arremangadas ahora en época de covid y siempre cuando desarrollan profesionalmente una tarea también

de actitudes que considero no están a la altura de la complejidad del tiempo que vivimos la incertidumbre que padecemos las dificultades que conocemos y vamos a seguir conociendo me refiero a la demagogia sin base con una acusación ventajista que obvia a la complejidad global y profunda de la situación la agitación interesada de la alarma social

la crítica de brocha gorda el todo vale los cambios de criterio con el único objetivo de desgastar al gobierno cuántas cosas se dijeron y se han dicho

realización de test capacidades y recursos de nuestro sistema hibernación de la economía atención sociosanitaria fallecimientos con covid transparencia el aplazamiento de las elecciones y su nueva convocatoria si fuera por euskal herria bildu y por elkarrekin podemos hoy no estaríamos aquí no sé ni si estaríamos en campaña electoral en precampaña sí permanente

le recuerdo que tenemos los ratios de alumno por aula más bajos del estado vamos a garantizar las medidas de seguridad en los centros este es el objetivo compartido apostamos por la educación presencial en el propio centro cuántas cosas se han dicho sobre las labores de búsqueda de alberto y joaquín en el vertedero de zaldibar

que afirma no se ha identificado la deposición de ningún residuo distinto de los contemplados en la autorización ambiental integrada

comprometimos una auditoría externa que afirma el departamento ha cumplido con los requisitos de inspección y control que establecen tanto la directiva de vertederos

comprometimos máxima colaboración con la justicia y lo estamos haciendo recuerdo que este tema sigue sub júdice lo cierto es que hemos autorizado

para reforzar las zonas de búsqueda vamos a seguir día a día repito

qué cierto es que el tiempo y las elecciones van poniendo cada cosa en su sitio es una lección aprendida serenidad perspectiva

en el rigor esto es en realidad lo que ha funcionado desde marzo hasta este momento este es el espíritu que va a mantener el gobierno ante los ingentes retos que afrontamos habiendo escuchado las

voy a detenerme un momento en responder sucintamente a cada uno de ellos señora martínez entiendo su estrategia usted necesita ser la portavoz de la estridencia en este parlamento sus palabras en realidad no están dirigidas a la sociedad vasca están pensadas para conseguir titulares en algunos medios de comunicación estatales

de caja de resonancia de su estrategia extremista no encontrará en mí señora martínez un aliado para alimentar su estrategia si se va a dedicar a la disputa permanente se encontrará con el vacío si quiere debatir encontrará la oportunidad de contrastar políticas y modelos

señora martínez la sociedad vasca ha hecho una apuesta firme y clara por una convivencia

del pasado que asuma nuestro pluralismo esto ha quedado reflejado en la distribución del voto que la voluntad popular ha ofrecido a cada fuerza política usted pide respeto a su formación política y a sus catorce mil votos yo le pido que no insulte

al resto de fuerzas políticas y sus electores iturgaiz jauna sentitzen dut baina zure hitzaldiaren edukiak

edo kornerrean no olvide señor iturgaiz que su partido está gobernando en un buen número de comunidades autónomas dónde está el hecho diferencial de la gestión del partido popular no abusemos de la demagogia estamos ante una pandemia

que afecta a todo el planeta a todas las comunidades estamos en un momento excepcional y la colaboración no debe tener siglas

en el diálogo y la cooperación entre las diferentes comunidades autónomas mañana viernes lo haremos una vez más le aseguro que compartimos las dificultades y prioridades

pertenecientes al partido popular presidentes de comunidades autónomas en el estado español y ciudades autónomas me han sorprendido sus referencias al inicio del curso escolar

y ha escuchado usted también en mi intervención propuestas y criterios claros para el inicio del curso escolar previsión coordinación y adaptación esta es una prioridad de nuestro gobierno pregunta usted por la agenda hoy he traído a este pleno

una agenda centrada en atender la crisis sanitaria garantizar los servicios públicos y con la prioridad del empleo y la recuperación económica es la agenda vasca señor iturgaiz esta es la agenda vasca en mi exposición

señor iturgaiz por razones identitarias mucho menos todo lo contrario nuestra apuesta es la cohesión social de una sociedad plural reconozco en su discurso sin embargo una parte propositiva y me quiero quedar con eso señor iturgaiz recojo sus propuestas en el ámbito de la prórroga de los erte por cierto modelo alemán

en la primera videoconferencia de presidentes señor iturgaiz el apoyo al comercio y al turismo los sectores industriales la estrategia sociosanitaria

en el fondo covid no sé si alguien ha reparado que para la liquidez de las pequeñas y medianas empresas

millónes de entrada que hemos dispuesto y estando dispuestos también a otros quinientos millónes más

no se han agotado los mil millónes por petición de las pequeñas y medianas empresas

como he dicho con anterioridad las comunidades autónomas compartimos necesidades y prioridades hernández jauna eta gorrotxategi andrea

son ejemplos de temas que responsables institucionales y políticos de su partido han venido a conocer aquí

en todo caso quiero subrayar que en la anterior legislatura tuvimos una experiencia de colaboración con la aprobación de los presupuestos dos mil veinte unos presupuestos que nos están permitiendo responder con eficacia a los retos que afrontamos

buscar aquellos campos en los que podamos colaborar de manera constructiva y efectiva por y para nuestra sociedad y sigo tendiendo la mano para ello he presentado propuestas he presentado prioridades he presentado iniciativas y están construidas desde una actitud de mejora continua de nuestra gestión por supuesto que tenemos que mejorar por supuesto

lo que no he escuchado de ustedes es propuestas o iniciativas que permitan mejorar la situación la complejidad del contexto actual pide algo más que lugares comunes tópicos y demagogia

usted señora gorrotxategi pone aquí en cuestión el sistema vasco de protección social es el sistema más avanzado del estado hasta tal punto que sirve de referencia insisto a las políticas estatales

cuestiona también nuestro sistema educativo cuando ofrece mejores resultados nuestro sistema educativo por ejemplo tenemos la tasa de abandono escolar más baja del estado

significa que tenemos un sistema equitativo le recuerdo también que la presión fiscal en euskadi es más alta y más progresiva que en nuestro entorno

agradezco al grupo socialista su intervención y su aportación a la experiencia del gobierno a lo largo de estos últimos cuatro años

suscribir el acuerdo que sustenta esta investidura un acuerdo de gran calado y concreción alcanzado en momentos de gran incertidumbre ante el futuro

tenemos diferencias cómo no ahora bien hemos demostrado capacidad para poner por delante lo que nos une en un contexto de incertidumbre y dificultad

ha utilizado su turno de intervención para hacer un balance de los ocho años

la tasa más baja del estado la renta por habitante más alta del estado tasa de riesgo de pobreza del doce coma uno por ciento

reconocidos por naciones unidas por nuestras políticas de cohesión social gasto en protección social por habitante de ocho mil setecientos euros

tasa de abandono escolar más baja del estado como he dicho y una de las más bajas de europa en todo caso el objetivo de nuestro programa es recuperar esta situación lo antes posible y contamos para ello con cuatro fuentes de recursos presupuesto aprobado

reordenación de prioridades presupuestarias y fondos europeos euskadi no está en la tercera división euskadi tiene problemas necesidades

cohesionado euskadi es un gran país ahora con una situación muy difícil pero con futuro usted lo ha criticado todo

o su modelo alternativo enseña mejor lo que más necesitan aprender en un país plural como el nuestro no se trata solo de ganar las elecciones

de setenta y cinco y terminan este debate con los mismos veintiuno votos su capacidad de forjar y sostener acuerdos sigue siendo inédita

en muchas de las intervenciones se han recogido visiones de carácter coincidente someto a su consideración la agenda de prioridades que plantea el gobierno las prioridades nos retratan son también una invitación a trabajar en común cada prioridad representa una oportunidad de colaboración con todos los grupos

el empleo es la mejor política social es nuestro primer objetivo volver a situar el paro por debajo del diez por ciento adaptar el sistema vasco de salud al reto de la covid refuerzo con rigor y evaluación de todos los servicios públicos y sociosanitarios cohesión social no dejar a nadie atrás

educación asegurar una educación presencial segura y de calidad digitalización integral del sistema educativo clima medio ambiente transición energética la sociedad de las instituciones y el tejido productivo estamos concienciados y preparados para convertir este reto en oportunidad

claves de la competitividad de la economía vasca acuerdo por la juventud que contemple los tres pilares de la emancipación formación empleo y vivienda nueva ley de juventud

promoción activa del uso del euskera convivencia basada en la igualdad el pluralismo y los derechos humanos memoria crítica del pasado y me dirijo en este sentido también a euskal herria bildu para recordarle que este gobierno ha sido el primero en plantear una nueva política penitenciaria acorde a la situación de la pandemia y ustedes lo saben bien

contamos con una base de acuerdo en este parlamento y tenemos una oportunidad por qué

porque es necesario un nuevo modelo de estado porque europa está en proceso de transformación porque nuestro sistema es singular porque debemos asentar la bilateralidad porque contamos con el modelo del concierto el concierto es un ejercicio de entendimiento y respeto entre diferentes

espero que todas las formaciones seamos capaces de interiorizar el significado real

la realidad es que hemos avanzado mucho en la ponencia de autogobierno y nuestro sistema debe ser actualizado después de más de cuatro décadas esta es una convicción compartida

de derechos de la ciudadanía en la dimensión social del autogobierno o en la mejora de la gobernanza interna de nuestras instituciones de autogobierno entre otros ámbitos

del modelo queda muy bien para el discurso populista de arengar a las bases pero no es creíble en términos de realismo político es bueno es saludable tener ilusiones y proyectos de futuro como pueblo como nación nadie ninguna opción política vasca cuestiona la bondad de avanzar en cotas de autogobierno responsable

que trae causa a su vez de la nación cultural de euskal herria la nación política no se limita al ejercicio de esos derechos históricos los derechos históricos

el hecho singular que nos permite ir creciendo como nación avanzando

las prioridades que he desgranado esta mañana insisto en que el reto es construir desde la diversidad de identidades acordar y pactar

ampliar ensanchar no se trata de renunciar a nada sino de acordar y pactar autogobierno es pacto y el marco está aquí en este parlamento

josu arantxa beatriz iñaki pedro

eguneroko lana benetan eskertzen dizuet soy consciente de la gravedad

tiene presencia mayoritaria un valor que invita a la cooperación y la colaboración esta va a ser nuestra determinación vamos a necesitar todo el apoyo y toda la ayuda lo digo con toda sinceridad y humildad comenzando por las instituciones

también en nuestra relación con el estado y europa ofrezco mi mano tendida y solicito la ayuda de la sociedad porque va a ser más necesaria que nunca la unidad y la colaboración solicitó la ayuda de las asociaciones agentes sociales y económicos el tercer sector

solicitó la ayuda a los grupos políticos y parlamentarios

más seamos capaces de colaborar mejor le irá a nuestra sociedad kezka eta zalantzen aurrean auzolana hori ere zuek erabili duzue

bueno dado que solo me permiten intervenir tres minutos y treinta y tres segundos en esta réplica me van a permitir que le traslade una respuesta conjunta a los dos candidatos no se puede apoyar a un candidato que desprecia la ayuda de la ume que prefiere tener a dos ciudadanos sepultados durante meses por un ideario nacionalista

no se puede apoyar a un candidato cuyo gobierno dice antes de las elecciones que la economía vasca va a descender por la crisis del covid diecinueve un ocho coma siete por ciento

de caída no dicen la verdad no se puede defender a un candidato que legislatura tras legislatura promete reflotar la margen izquierda y año tras año está más deprimida no quieren ayudar

sin cerrar antes la tajada a obtener no es solidario

cuyo partido tejió la alianza en lizarra para salvar a eta

no es moral no se puede apoyar a un candidato que divide a la sociedad vasca en buenos y malos vascos según la lengua que hablen no se puede permitir no se puede votar a un candidato cuyo partido no asume la responsabilidad de años de corrupción de financiación ilegal de haber convertido a álava en la casa de una mafia al estilo siciliana con el caso de miguel

no se puede apoyar a un candidato que en campaña reniega de los cordones sanitarios y los practica cuando alguien no comulga con su ideario no es leal ni es

no se puede votar a un candidato que destina más tiempo a tejer sus áreas de influencia que a diseñar protocolos escolares

no es de recibo no se puede votar a un candidato que ostentando la representación del estado en la autonomía dice sentirse solamente vasco

no se puede apoyar a un candidato que propone un gobierno bicéfalo y que firma pactos secretos con sánchez con nocturnidad y alevosía no se puede consentir
saben qué repártanselo ustedes eskerrik asko martínez andrea

me gustaría señor urkullu hacer dos apreciaciones si me lo permite además el tono tono diferente a otros lehendakaris que he tenido la posibilidad de escuchar

mire usted los erte fueron incorporados en la reforma laboral

lo recordará en la reforma laboral del partido popular

que ustedes el partido nacionalista vasco aquí la votaron en contra en este parlamento vasco sí sí en este parlamento vasco y que el partido socialista de euskadi con podemos y con bildu con ese frente de izquierdas

afortunadamente no han logrado derogar antes de la pandemia porque si no

para miles y miles de personas que lo necesitan en nuestra tierra como en el resto de españa otra apreciación sobre el tema de zaldibar hemos traído un informe

que estaba hablando de indicios de criminalidad u otro informe de la unión europea del comisario de la unión europea donde

del comisario estaba diciendo que hay indicios también de que no se tomaron las medidas medioambientales oportunas

y la cuestión de zaldibar el problema de zaldibar fue que no se hizo investigación no se informó no se inspeccionó como se debía hacer en zaldibar y que no eran improvisaciones como le decía el consejero

realidades que desgraciadamente hoy como le he explicado anteriormente tenemos lo que tenemos en zaldibar con todavía una persona desgraciadamente bajo los escombros

yo hubiese comenzado en estos momentos de otra manera pero después de escucharle a la señora

yo creo ella lo ha dicho muy alto muy claro e incluso

pero le recordaba las vergüenzas del partido nacionalista vasco y lo ha aclarado

esos pactos sobre el estatuto sobre el nuevo estatus que siguen siendo pactos

que lo que quieren presentar es más autodeterminación más derecho a decidir y que lo tenían

en la vía del tren con ustedes con el partido nacionalista vasco por eso señor urkullu yo le digo la sociedad vasca de nuevo

la sociedad esta sociedad se mueve se mueve siempre

escondidos o pactos interesados con determinados grupos políticos el nuevo estatuto no es la preocupación de los vascos cuando se levantan por la mañana ni tampoco piensan los vascos si necesitamos más autogobierno o menos autogobierno

las verdaderas preocupaciones los problemas reales de los ciudadanos se están centrando en estos momentos usted sabe primero no enfermar

y los que están enfermos que quieren sanarse cuanto antes

en nuestra sociedad quieren encontrar lehenbailehen lo antes posible un puesto de trabajo

y los que están trabajando lo que quieren y lo que pretenden es volver lo antes posible a esa normalidad a esa rutina que tenían antes del mes de febrero o el mes de marzo por lo tanto cuando

solo piensan si se puede salir de esta crisis si es que hay luz

subir la persiana de sus comercios tantos y tantos comerciantes que no saben si van a tener que abrirla o cerrarla esa persiana

tantos y tantos autónomos que tienen gravísimos problemas y esos son los verdaderos problemas de esta sociedad

principalmente usted está angustia por lo que está ocurriendo en estos momentos

la realidad es que tenemos una sociedad diferente a hace cuatro años lógico e incluso a hace ocho meses pero su discurso mire no ha cambiado nada insisto cero autocrítica se lo he dicho antes señor urkullu

sin compromisos mucho deseo mucha aspiración mucha intención como le decía etcétera etcétera en definitiva mucho bla bla bla pero por cierto sobre

de educación son las quejas que nos plantean ayer mismo todavía las quejas de los agentes educativos

que también en los medios de comunicación que aparecen porque los medios de comunicación también hablan con los mismos agentes educativos es que son esos agentes educativos los que nos están trasladando esas quejas pero sus recetas son se lo decía anteriormente las del pasado las del fracaso de la gestión la improvisación la ineficacia usted lleva ocho años gobernando y traen casi aquí

muy amplia para usted que por cierto ese es el programa que ustedes no han cumplido mucho de ello

ahora nos hablan de veintiséis leyes usted prometió en esta cámara veintiocho leyes en su programa legislativo sí sí señor urkullu lo hemos leído los tenemos ya se las pasaré

cuántas ustedes han aprobada aquí en esta cámara ocho leyes

otras personas otros partidos políticos la sociedad cambia y usted no cambia

quería hablarle del tema otra vez del autogobierno que lo ha citado

de mi intervención yo le quiero dejar claro nuestra posición la del grupo popular y ciudadanos es la defensa

del estatuto se deben reformar las que se quieren conservar se deben reformar las que se quieren conservar y aquí viene el quid de la cuestión ustedes los nacionalistas no quieren conservar este estatuto de gernika sino que usted quiere ustedes quieren

de casa tú no acometes obras de reforma y de mejoras para qué si la vas a vender si te vas a cambiar

es que ustedes sí quieren cambiar de casa quieren cambiar de casa con estos señores por eso no quieren reformas en este estatuto y el cambio de casa

que sirve para la independencia del país vasco y para la anexión de navarra yo se lo respeto perdón yo se lo repetía a la sociedad vasca en campaña hasta la saciedad

con la careta de la moderación que ustedes iban a aparcar en un cajón el tema del estatus y que lo iban a sacar lo iban a volver a sacar pasadas las elecciones se lo dije también en el debate yo

batido récords de velocidad enviaron como ariete a la señora presidenta a anunciarlo la presidenta del parlamento a anunciarlo en su discurso y ustedes ya van a estar en la locomotora en marcha van a poner la locomotora en marcha de ese

la realidad es que los nacionalistas el nacionalismo en general siguen buscando ustedes esa puerta

de la constitución la puerta de salida del estatuto

y ustedes se tunean magníficamente y pasan de la moderación a la radicalidad cuando ustedes quieren

y en algunos momentos están en esta moderación y nos venden la moderación y otros momentos ustedes se van a la radicalidad

cantarnos canciones de mikel laboa y luego se van a madrid y pues nos cantan a manolo escobar pues muy bien el partido nacionalista vasco es así es así tienen ese juego que les va bien en determinados momentos y como les decía anteriormente

una cosa es la reforma del estatuto y otra bien distinta posicionarse en clave en clave señor urkullu de voladura de la constitución española

hablando usted de bilateralidad cuando usted quiere sobre todo unilateralidad y no bilateralidad por cierto un apunte ya que

yo para decirle que no hay nada más español que la foralidad y si no

revise la historia de dónde viene y aprendan que no hay nada más español

acuñando la frase mano tendida a la colaboración yo le digo mal comenzó escondiendo a la opinión pública y a la oposición a toda la oposición

para que no lo destroce la oposición por cierto señora mendia

el que ustedes escondieron y que no lo enseñaron hasta hoy hasta que nos hemos sentado los parlamentarios en los escaños de este parlamento la capacidad de estar atento al debate y de leerlo le aseguro que para mí es muy complicado es muy complicado ahora yo no sé yo tal vez yo sé mis limitaciones yo no no si yo sé mis limitaciones muy bien ahora

perfecto pero hablemos de una cuestión nosotros sí leímos las bases ese papelín de cinco páginas pero no desvíe la atención señora mendia el problema

de cómo dijeron los medios de comunicación que ustedes en el tema del estatuto lo aparcan usted lo ha dicho aquí se desmarcan lo dejan como una cuestión que no va con ustedes porque no van a llegar a ese acuerdo con el partido nacionalista vasco afortunadamente pero les deja vía libre

para que en ese momento cambie de pareja de baile y se vaya con esa señora

mendia para finalizar señor urkullu ha citado

ocasiones también que nos tiende la mano y luego no sé nos la desprecia yo no sé si así quiere construir entablar lazos con la oposición

y luego ofrece puño puño de hierro pero yo quiero decirle para terminar que el grupo partido popular ciudadanos insisto para salvar vidas en este país

para generar empleo estaremos apoyándolo en todo absolutamente en todo

para arruinar euskadi entonces usted tiene que mirar enfrente de su bancada y tendrá que hablar con la otra candidata

si usted lo que quiere es arruinar euskadi con los de bildu muchísimas gracias eskerrik asko iturgaiz jauna

erantzutea baina gauza bat gura dut esatea mire señora martínez es indudable que ustedes tienen legitimidad democrática porque han obtenido a través de los votos un escaño esos votos y ese escaño entre otras cosas los avala el estatuto de autonomía de gernika y la constitución española

con un carácter y con unos principios democráticos por parte de su partido

le voy a advertir ya le adelanto lo que va a ver desde su escaño en esta legislatura

aprobará leyes que protegen servicios públicos que devuelven la dignidad a todas las víctimas de todas las injusticias verá y van a oír hablar de igualdad van a ver cómo se construye una sociedad que no distingue en función de su origen de su sexo de sus creencias o de sus pensamientos

ojalá que aprendan algo de eso para conseguir adquirir algo de carácter democrático mientras tanto solo les voy a decir que me siento muy orgulloso

al señor iturgaiz tenía pensado darle la bienvenida por su regreso al parlamento pero he cambiado de opinión y he decidido darle la bienvenida al futuro porque lo que ahora para todos nosotros es presente para usted es futuro

con el mismo discurso que tenía hace veinte años y qué quiere que le diga escucharle afortunadamente me rejuvenece

afortunadamente euskadi ha cambiado mucho muchísimo desde que usted abandonó este parlamento para emprender

en europa y si ha cambiado entre otras cosas ha sido por el esfuerzo democrático de esta sociedad y de muchos partidos entre otros el nuestro que está representado en esta cámara y tengo que decirle que ha habido muchas cosas que le he escuchado que no me han gustado en absoluto porque me han parecido una falta de respeto hoy

a las cuevas de ekain y con sugerencias como que en euskadi

muchísimos chiringuitos creo que usted ha faltado al respeto a muchas personas que desde eso que usted denomina chiringuitos por compromiso con esta sociedad se han jugado la vida y creo que es una falta de respeto lo que ha dicho en cualquier caso si usted quiere saber lo que es un chiringuito descuelgue el teléfono llame a esperanza aguirre a santiago abascal

usted ha hablado de mano tendida de acuerdo entre diferentes de trabajo conjunto de unidad yo le pediría que volviera a descolgar el teléfono y que hablará con su compañero pablo casado

al gobierno de españa a ese trabajo conjunto al que usted reclama en definitiva yo le sugeriría que dejara a un lado el revanchismo y la indigestión de una moción de censura que parece que todavía

y ya sé que evidentemente es muy complicado leer estas noventa y uno páginas mucho más redactarlas y hacerlas posible en un acuerdo entre diferentes

y el partido nacionalista vasco pero yo le sugiero que lo lea que lo lea con atención y que antes de leerlo se tome un omeprazol

que no le van a gustar por qué porque en este programa se habla de empleo estable digno de reactivación económica de pymes de emprendizaje de ayuda a autónomos de erte

se habla del refuerzo de los servicios públicos del fortalecimiento de los mismos

de educación pública de que todo el mundo tenga derecho acceso a una educación y

se habla de desarrollo rural se habla de turismo sostenible se habla de defensa del consumidor se habla de la vivienda como un derecho subjetivo se habla de inclusión social de no dejar a nadie atrás de conciliación real de oportunidad para nuestros jóvenes de lucha contra la violencia machista de igualdad de cuidados

de euskera de nuestra cultura de tantas y tantas cosas que ustedes no hacen

autonómicos que lideran una última cuestión señor iturgaiz efectivamente no hay nada más español que la foralidad pero tampoco hay nada más democrático que los derechos y libertades y en eso afortunadamente nosotros les sacamos un trecho a elkarrekin podemos y a la señora

decirle que han sido los perfectos aliados de eh bildu que se han pasado durante toda la campaña electoral hablando de un tripartito que hoy ni tan siquiera ha merecido sus votos

ha expuesto aquí su programa de gobierno

somos más de lo mismo de ese partido que está gobernando con ustedes en madrid y que está haciendo posible tantas políticas sociales en fin ustedes en definitiva solo han servido

a un camino sin destino a un camino sin ninguna parte solo les deseo que sus turbulencias orgánicas terminen y que de alguna manera tengan la estabilidad interna para poder llegar a acuerdos con otros partidos en esta cámara sin verse cautivos a otras cuestiones señora iriarte iriarte

lidergoa aldarrikatzera argi eta garbi dago ha dicho que somos un gobierno

para que un gobierno tenga rumbo hace falta proyecto y ese proyecto está aquí es el acuerdo de gobierno entre el partido nacionalista vasco

que afortunadamente vamos a garantizar ambos partidos y que va a hacer posible que este acuerdo de gobierno y las políticas sociales que hay en el mismo salgan adelante a mí lo que sí me gustaría saber es si usted tiene cuantificados los gastos que derivarían de su programa de gobierno y de dónde sacarían los ingresos estoy convencido que si hoy en un triple mortal con tirabuzón todos nos volviéramos locos y le hiciéramos a usted lehendakari le daríamos uno de los mayores disgustos de su vida

nos preguntaba qué es lo que nos preocupa lo que nos preocupa está aquí están en sus objetivos en los objetivos de este programa de gobierno y en las soluciones que proponemos la sanidad la educación el empleo la innovación la igualdad

en definitiva llevar a cabo sacar adelante este gobierno su solución ya sabemos cuál es porque es la vieja receta derecho

dada la situación mucho menos no es en absoluto una prioridad para la ciudadanía vasca zuek iriarte andrea ametsetan guk beti

expresión de soberanía que la de hoy poder elegir al lehendakari que liderará el próximo

como la pasada legislatura que parezca que hay más de un gobierno para usted gobierno solo habrá uno evidentemente habrá discrepancias porque afortunadamente en democracia

pero discreparemos desde la lealtad desde esa lealtad que ha hecho posible que también en este acuerdo de gobierno estén reflejadas nuestras discrepancias en cualquier caso ustedes también son expertos en eso porque muchas veces han discrepado con el partido nacionalista vasco y no han tenido

de reparos en llegar a acuerdos con ellos cuando de cuestiones soberanas se refiere usted apelaba a una mayoría social y política no vale únicamente la que ustedes reivindican hacen falta acuerdos de país y en eso efectivamente estoy muy de acuerdo con ustedes

sin ustedes porque nunca han participado en ningún gran acuerdo de país y a pesar de ustedes y a buen entendedor

acuerdos y una vez más si llegan llegarán tarde y llegarán

no lo han sido como la pasada legislatura con un gobierno en minoría

para llegar a un acuerdo presupuestario que a última hora no tuvo su refrendo porque ustedes se rajaron qué quieren que le diga nunca una renta

va a ser tan irrelevante en la historia política de este país reclaman rumbo determinación proyecto diálogo

partido socialista obrero español baina baita ere gara

para tener credibilidad hacen falta hechos no palabras y usted aquí ha dicho que le gustaría que se reconociera

estoy muy de acuerdo con usted y comparto esa reflexión pero para respetarlas primero hay que condenar todas las violencias espero y deseo que durante esta legislatura escuchemos de su boca esa condena porque creo que sería

en este país en los últimos años afirmaciones como hechas

les daría credibilidad creo que ya va siendo de que lo hagan por nuestra parte y con esto finalizo tendemos la mano al acuerdo

al consenso que haga posible salir de esta crisis y de esta situación egonkortasuna herri honekin konpromisoa

euskal herria bildu en ningún momento cuestionó la legitimidad del gobierno vasco en funciones para liderar este país señor urkullu

fuimos las primeras en pedir un aplazamiento de las elecciones y no precisamente en modo alguno para realizar las elecciones

de un lado el debate electoral y partidista para poder centrarnos en lo que realmente era importante propusimos crear marcos de encuentro políticos y sociales

de forma conjunta la respuesta del partido nacionalista vasco fue el más absoluto desprecio

y señor urkullu no es euskal herria bildu quien le ha dicho

la decisión de convocar las elecciones en julio fuera improcedente o no sino que ha sido la propia ciudadanía a través de las encuestas y sobre todo ante la masiva abstención

es también culpa de euskal herria bildu que la mitad de la ciudadanía no haya ido a votar sabemos que para el partido nacionalista vasco la autocrítica es la crítica que tiene que hacer eh bildu sobre las actuaciones que hace euskal herria bildu

sobre las actuaciones que se tienen que hacer cuando las cosas se ponen difíciles usted su partido

también deberían de realizar autocrítica sobre cuál es la actuación que ha realizado mencionaba también el curso escolar no le ha gustado

comentara las preocupaciones que en el día a día que en el día a día las que somos padres madres abuelas abuelos pero las que nos encontramos en general han puesto encima de la mesa no le han gustado usted ha dicho que va a garantizar el curso escolar

y no lo ha dicho euskal herria bildu lo dicen los sindicatos convocando una huelga pero también lo han dicho los directores de los centros educativos cuando después de la

la señora uriarte decían que estaban peor que antes o cuando le decía como le señalaba

se dirigen a los padres y a las madres diciéndoles que ustedes les han dejado solos yo misma he recibido tres notificaciones en tres días del centro escolar en el que estudian

cada día con planteamientos diferentes pero eso también debe ser culpa de los centros educativos zentzu horretan